buenos días gracias señora presidenta la institución del ararteko es sin duda una de las mejor valoradas no solo por los ciudadanos

al que asiste con la elaboración de sus informes en los que refleja la realidad acerca de los temas de la actualidad

para darse cuenta de su actividad y el reflejo que eso tiene en el día a día de la sociedad vasca sin embargo todo ese trabajo que se ha desarrollado

que nuestro grupo no puede dar por bueno y menos en la situación actual de necesidad en esa necesidad de reducir gastos y muy especialmente en ese capítulo

se ha producido una polémica a la hora de aprobar el presupuesto del ararteko por cuanto

comisión en la que se aprobó el presupuesto de esta cámara considerábamos que hay un excesivo número de personal de confianza

que sería necesario el revisar el evaluar para ver si está equilibrado en relación con las funciones que tiene dicha institución

en aquella comisión el partido popular manifestó su intención de proponer una reforma legal porque lo que sí nos dimos cuenta era que debía ser la propia institución el parlamento el que abordara esa reforma legal no debíamos dejarlo en manos del ararteko sino que debería ser esta institución de la cual depende la que abordara

lo que hasta ese momento se estaba produciendo de una manera desordenada y sobre todo porque

desde nuestro punto de vista es que la buena labor del ararteko el buen hacer del ararteko que yo creo que en este último tiempo ha tenido un impulso muy importante

por una polémica de su organización interna

a presentar una reforma legal una propuesta de reforma legal de la ley del ararteko

motivó la presentación de esta proposición de ley nuestra propuesta dentro de esta proposición de ley lo que plantea es que

se someta a votación dentro de la comisión de instituciones interior es decir que sea el propio ararteko el que formule una propuesta de reglamento que sea analizada

para que de esa manera quede refrendada por esa mayoría del parlamento y podamos cerrar esa polémica que desde luego en nada beneficia a la institución

sin embargo cuando estábamos elaborando esta reforma legislativa fuimos conscientes de que ya en el parlamento se había hecho un trabajo en el año dos mil seis una ponencia que se abrió en el seno de este parlamento

las posibles reformas que necesitaba el ararteko en aras a afianzar su independencia

eficacia a la hora de desarrollar el cometido que tiene por mandato de este parlamento esa ponencia estuvo trabajando entre los años dos mil seis y dos mil ocho y en el dos mil ocho cuando ya tenía elaborado un dictamen que se convirtió en una proposición de ley con propuestas concretas de modificación

la legislatura y con todo el respeto por el trabajo realizado por esa ponencia

esas conclusiones esa reforma legislativa que fue aprobada y que fue consensuada por una mayoría de esta cámara quisimos

porque considerábamos que estaban de actualidad esas reformas que se planteaban

después de la aprobación de esta proposición de ley y que podía ser la oportunidad también por el momento en el que nos encontramos en ese

próximo nombramiento en su caso de un nuevo ararteko que pueda comenzar a trabajar con una nueva legislación en unas nuevas circunstancias que pueden facilitar

es decir que la institución del ararteko tenga una regulación que beneficie su trabajo de cara a la sociedad en su independencia

contiene esta proposición de ley podemos dividirlo en tres bloques tal y como han podido leer en la proposición de ley un primer bloque que

con el mismo procedimiento que el requerido para el ararteko un segundo bloque de modificaciones que tienen que ver con cuestiones que afectan al estatuto de funciones derechos y potestades del ararteko como los relativos a la objetividad y parcialidad en el funcionamiento régimen jurídico acceso directo

algo que ya se está haciendo como bien recuerda el informe de facto pero que no está recogido de una manera explícita en la propia ley que regula el ararteko y un tercer bloque que serían ya modificaciones de carácter técnico más aclaratorias ante posibles lagunas o interpretaciones de la actual ley

y mejor funcionamiento de la institución del ararteko al incremento de las garantías en definitiva de los ciudadanos como les digo señorías

para presentar esta proposición de ley no solo para evitar la polémica que continuamente se estaba produciendo en cuanto al sobredimensionamiento

con esas treinta y ocho personas que están designadas

que nos parece que es excesivo y que en cualquier caso merece dar una vuelta y que precisamente sea esta institución el parlamento el que a través de la comisión de instituciones interior

el momento idónea por lo que les decía porque se abre una nueva etapa con un nuevo
ararteko isiltasuna mesedez en las próximas fechas que puede facilitar

su trabajo en los próximos años y darle una garantía y una estabilidad que es necesaria para esta institución

por lo que he podido conocer saldrá adelante esta proposición de ley y

en esta cámara creo que será en esa ponencia que se crea a partir de hoy en la que podamos trabajar ojalá lo hagamos con la celeridad suficiente para que los tiempos vayan acompasados y que el nuevo ararteko cuente también con una nueva legislación muchas gracias

hay explicación de voto ahora bai es que hemos hecho otras veces

ahora

yo propondría si se deja las votaciones para el final de la mañana por la ausencia de algunos parlamentarios
hagamos también en ese momento en su caso explicación de votos no ahora otra vez hicimos

explicación de voto maneiro

y a todos a pesar de que todavía no hemos votado es el momento también de anunciar que en mi caso concreto voy a abstenerme

abstenernos o voy a abstenerme porque votar a favor

que validamos la institución del ararteko y ciertamente tenemos serias dudas de que no debamos suprimirla al menos consideramos indispensable reflexionar sobre esta posibilidad y estudiar posibles alternativas creo que de aquí a los próximos meses en los próximos años este debate también debería producirse el presupuesto

de euros el presupuesto se ha elevado de tres a cuatro coma cinco millónes de euros en los últimos años es decir se ha incrementado en un cincuenta por ciento en la última década

tiempo en un veinticinco por ciento ha pasado de cuarenta a cincuenta trabajadores en concreto la plantilla la forman a día de hoy cuatro personas en el equipo directivo dos de asistencia de asistencia a la adjunta diecisiete técnicos asesores tres responsables de las oficinas de atención ciudadana

servicios administrativos el ararteko que es aforado
tiene un sueldo de ochenta y seis mil euros es decir isiltasuna mesedez el ararteko

es decir cobra en la actualidad más que el presidente del gobierno

es también extraordinariamente elevado el ararteko tiene decenas de asesores treinta y uno asesores y el personal de confianza que incluye un chofer alcanza los diecisiete funcionarios en todo este tiempo la cifra de quejas se ha multiplicado por tres y los expedientes han crecido un ciento veintitrés por ciento el ararteko a día de hoy elabora informes extraordinarios

realiza todo tipo de estudios y mantiene múltiples reuniones con asociaciones

las preguntas que nosotros queremos realizar para que al menos sirvan para la reflexión son las siguientes es necesario que esta institución elabore todos los informes extraordinarios que elabora o que redacte todas las recomendaciones generales que habitualmente ha venido

no hay alternativa a una institución de este tipo es necesario que cada comunidad autónoma tenga su propio defensor del pueblo es indispensable que

semejantes no hay alternativa a lo que tenemos y en todo caso estamos pensando en una alternativa que obviamente pudiera funcionar de la mejor manera posible

nosotros planteamos algunas alternativas una posibilidad es que se mantenga la defensoría nacional y que esta tenga delegaciones en las distintas comunidades autónomas tal como el propio gobierno de españa ha planteado en los últimos tiempos se llevó a cabo un informe elaborado por el propio gobierno de españa a impulso del gobierno de españa donde se señalaba expresamente

anuales en total en el caso de que se suprimieran los defensores del pueblo autonómicos y en el caso de que esa labor la realizará la defensoría nacional creo que es un estudio ciertamente riguroso que al menos deberíamos tener en cuenta dado que su función primordial es salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de autoridad y poder y la negligencia

otra opción podría ser que hubiera una comisión parlamentaria del tipo que se ha puesto en marcha en asturias una comisión

regional que llevar a cabo esa labor al fin y al cabo esa es la labor que corresponde a los representantes de los ciudadanos defender los intereses de estos

y desde luego mejorar el trabajo parlamentario y de los representantes políticos impulsar nuevas medidas de transparencia permitir más participación ciudadana hacer que las instituciones funcionen mejor no olvidemos que el ararteko

y obviamente que la justicia funcione mejor de manera más ágil y que sea más independiente estas son las posibles alternativas que nosotros planteamos a lo que existe a día de hoy dicho esto tengo que reconocer y decir que

de ley planteada por el grupo popular plantea una serie de modificaciones que nosotros vemos bien

se pretende por parte de este parlamento suprimir esta institución lo que plantea el partido popular consideramos que son modificaciones apropiadas en concreto

que las quejas puedan llegarse a responder en veinte días o que

interno del organismo nos parecen modificaciones que son interesantes pero nosotros queremos ya digo abrir un nuevo debate si no hay alternativas a la institución

y se sientan mejor representados al menos es necesario pensamos nosotros abrir ese debate termino diciendo que en todo caso tomada en consideración

sea más eficiente y funcione mejor y desde luego mientras siga existiendo es indispensable reducir su estructura y redimensionarla

y el personal de confianza es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo

sí si se me permite desde el escaño yo seré un poco más breve que el señor maneiro

nosotros hemos votado votaremos a favor de la toma en consideración otra cosa distinta será la posición que mantengamos cuando se discuta definitivamente

que después de veinte años necesita evidentemente una actualización bien está que pongamos en marcha un análisis y un estudio sobre esa actualización

quien presente esta iniciativa y bien está que sea precisamente el partido popular

los defensores del pueblo autonómicos nosotros pensamos que el ararteko cumple una función importantísima en nuestra sociedad que tiene posibilidades de mejora

que es el que se esgrime no puede ser el elemento que se ponga encima de la mesa para justificar su desaparición porque según ese mismo argumento

también podríamos disolver todos los gobiernos autonómicos porque seguro que ahorraríamos bastante más que disolviendo el ararteko esto es una concepción del estado que nosotros no compartimos en absoluto

a la hora de dar el visto bueno a esta toma en consideración eskerrik asko pastor jauna

de la figura del ararteko defendemos de modo global su actividad y creemos que es una institución útil

creemos que debe profundizar en ser un contrapeso independiente al resto de instituciones y defendemos que es imprescindible encontrar una figura de consenso

encaminados a mejorar y a actualizar la normativa que regula la institución del ararteko dicha labor que obtuvo un gran consenso no pudo ser aprobada

retomar como base el documento que gozaba de amplio acuerdo de los grupos entonces representados en este parlamento acuerdo y consenso que no se ha buscado para nada

ikusita akordioaren aldeko lanak esfortzu gehiago merezi izango zuen nos parece que hubiera sido cuando menos más elegante presentar una iniciativa hablada acordada con el resto de grupos no nos parece la mejor forma de modificar la normativa que regula una institución de la importancia del ararteko mediante anuncios ante los medios de comunicación

a la institución como a los trabajos realizados por la mayoría de los grupos parlamentarios también hoy presentes en esta cámara

han surgido comentarios contrarios al número de personas y asesores que tiene la institución así como a la forma de elegirlas

planteado por más de un grupo por lo que nos ha extrañado que no se haga ninguna mención al respecto en la proposición de ley presentada también se ha suscitado el debate respecto a lo que cobra el ararteko cuando en esta cámara existen parlamentarios que también

muchas gracias presidenta señorías

que el gobierno no cree en los empleados públicos y podemos decir esto porque llevan tres años sordos y ciegos ante las propuestas sindicales para hacer una ley de empleo público

haya tenido que devolver al cajón el anteproyecto elaborado sin siquiera haberlo traído al parlamento

la totalidad de los sindicatos del sector público el cinco de noviembre y esta parálisis a la altura de la legislatura que llevamos nos hace temer lo peor

euskadi necesita modernizar su administración y adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de los ciudadanos para ello necesita también adaptar las condiciones en las que deben trabajar los que hacen posible esos servicios públicos

el tren de la modernidad en esta materia el lehendakari incluyó esta ley en el calendario legislativo que presentó al inicio de su mandato

y se puede ser flexible con ese calendario podemos defender además

preferimos que este proyecto de ley llegue consensuado con los agentes sociales antes que tenga entrada en este parlamento lo que no podemos aceptar es que aún los sindicatos

los mismos a los que pidieron aportaciones al día de hoy no tengan una respuesta llevan esperando desde el cinco de noviembre la última vez que se reunió la mesa

se comprometieron a presentar un borrador de ese texto para primeros de diciembre por eso arrancamos el período de sesiones como lo terminamos

pleno de control el doce de diciembre le pregunté al consejero en una interpelación

que solo había pasado un mes desde la mesa sectorial y no habían podido estudiar todas las alegaciones cuál es la excusa el cinco de febrero

que el departamento tiene en sus manos centenares de aportaciones sindicales desde el cinco de noviembre

se comprometió a ofrecer una propuesta articulada del borrador antes del cinco de diciembre y hoy cinco de febrero todos seguimos esperando

que demandan servicios ágiles que deben prestar esos empleados como no sabemos la excusa estamos convencidos de que el análisis que hicimos fue

porque no ha tenido en cuenta que esta ley debe regular una materia que afecta a decenas de miles de trabajadores públicos para adaptar sus funciones a las necesidades de los ciudadanos y que se habían pasado por alto contar con la colaboración de los representantes

hoy no saben cómo encajar las propuestas sindicales o no quieren hacerlo este gobierno se ha sentido muy cómodo con la ley básica estatal

este gobierno que tanto gusta de protestar por el abuso competencial que suele hacer el ejecutivo central se muestra sumisa ante lo que establece

en diciembre cuando presenté la interpelación que da lugar a esta moción

la profunda preocupación que tenemos los socialistas sobre la falta de ideas que vemos en este gobierno para poner al día el conjunto de la administración y hacerlo de la mano de quienes representan a más de cien mil trabajadores hoy tenemos que lamentar

se confirmen solo hay que mirar lo que está pasando en lugares tan sensibles como la sanidad o la seguridad los sindicatos confirman en todos los casos

posteriormente la falta de diálogo social diálogo social sentarse en una mesa para sacar unas fotos postergado dos años los acuerdos con los agentes sociales para emprender medidas a favor de empleo diálogo social

los gobiernos si quieren que aquello que gestionan responda a las necesidades de los ciudadanos y es evidente que este gobierno no tiene práctica en esta materia

ha puesto en pie de guerra a todo el sector público y no es capaz

si quiera en el ámbito de su exclusiva competencia no se recuerda tanta unidad sindical en euskadi y ustedes han conseguido que haya sido posible

frente a las intenciones de este ejecutivo no quiero entrar en este debate

el de elaborar el plan de empleo a medio plazo que garantice el relevo generacional en la administración pública de esto hablaremos en pocas semanas porque hemos presentado

decide por parte del gobierno tampoco de los contenidos de esta ley de empleo público si llegara a remitirse a este parlamento sería cuando los grupos debamos pronunciarnos

lo que queremos es reclamar la previa es decir y no queremos más excusas ni demoras quienes creemos en el empleo público en los miles de trabajadores y sus derechos en el trabajo de los médicos o ats que nos atienden en los ertzainas

en los maestros que educan a nuestros hijos urgimos la elaboración de esta ley quienes creemos que esos trabajadores son los agentes imprescindibles

que son garantía de igualdad y de cohesión social defendemos una regulación de las condiciones laborales a lo que hoy demandan los ciudadanos y es evidente

que deben prestar los servicios públicos hasta el día de hoy ni les contestan y ello es una muestra

ante tantas dudas y tanta desconfianza este parlamento

de esos servicios debe reclamar al gobierno un calendario de negociación con los representantes de los trabajadores nosotros creemos es que es importante

antes de que finalice el actual periodo de sesiones es verdad que el gobierno

del año pasado obviamente ya ha pasado ahora su previsión es

de este año pero tan cierto como esto es que los sindicatos aún no han recibido ni siquiera sus alegaciones y que el ejecutivo ha incumplido

eso nos hace dudar de la voluntad real de este ejecutivo y este parlamento quiere ya

plazos y compromisos para hacer realidad la actualización de las condiciones en las que decenas de miles de trabajadores garantizan los servicios públicos

hemos presentado esta moción como consecuencia de interpelación efectuada ante este pleno el doce de diciembre

porque consideramos necesario que se elabore ese calendario de negociación del anteproyecto de ley de empleo público vasco

que esta vez se cumpla que la ley de empleo público vasco llegue a este parlamento también consensuada con la representación sindical de los trabajadores en la mesa

antes del treinta de junio del dos mil quince esto es antes de que finalice el actual periodo de sesiones

el acuerdo que se adoptó dentro de esta cámara el trece de noviembre en el acuerdo monográfico sobre el empleo y la pobreza

que ha realizado el grupo eh bildu no

presentar o estamos presentando en este momento la enmienda transaccional porque este punto iba a ser el tercero y ha sido adelantado al segundo pero

presentarse esa enmienda transaccional firmada por el partido socialista y el grupo eh bildu porque consideramos que es importante

que se cumpla de una vez y que la ley de empleo público en este segundo plazo que se da el actual gobierno vasco se cumpla

la ley de empleo público negociada y se presente antes del treinta de junio de dos mil quince en esta cámara

estudiarla y presentar las enmiendas correspondientes nada más y muchas gracias

sí muchas gracias recalca el grupo socialista con razón que el anteproyecto de ley de empleo público vasco es una norma de gran importancia dado que una vez aprobada

del ejecutivo diputaciones y ayuntamientos y reclama una verdadera negociación entre las partes esto es ejecutivo y sindicatos que no se estaría dando presente y a partir de ahí y con este argumentario presentó la moción correspondiente que ha dado lugar a esa transaccional que todavía no hemos tenido oportunidad

durante la interpelación el grupo socialista realizaba un relato histórico de los hechos acontecidos durante los últimos meses

mantuvo en la mesa de la función pública el pasado día once de septiembre de dos mil catorce y explica que a partir de ahí

que están perfectamente explicadas en esa interpelación el cinco de noviembre de dos mil catorce se reunía de nuevo la mesa de la función pública en la que participaban el viceconsejero de función pública ela comisiones obreras ugt y lab

de distintas alegaciones y el compromiso adquirido por parte del ejecutivo de presentar un nuevo texto antes del cinco de diciembre cosa que

el grupo socialista en aquella interpelación realizada el pasado día doce de diciembre el señor consejero decía cosas que podemos

no solamente es propósito del gobierno o más bien desear decía que no solamente es propósito del gobierno llevar acabo una negociación real efectiva y verdadera en relación con este anteproyecto de ley además esa negociación se está desarrollando y decía el consejero que el texto que está en circulación en este momento no sale unilateralmente del gobierno sino de un equipo de trabajo constituido en septiembre de dos mil trece

de dos mil catorce y señalaba que se habían contabilizado

alegaciones de las cuales cuatrocientos veintisiete fueron presentadas por los diferentes sindicatos y aseguraba el señor consejero que es propósito del gobierno responder a todas las alegaciones y avanzar en el proceso negociador del mes de enero por su parte el grupo socialista insistía en que hasta ahora no se ha contado con la opinión de los sindicatos simplemente se han presentado una serie de alegaciones argumentos que ha reiterado hoy la portavoz

el señor consejero señalaba que el texto está siendo objeto de modificaciones por tanto se está produciendo una verdadera negociación real y con contenidos y terminaba pidiendo tiempo hace falta tiempo decía

en dos días nosotros compartimos los argumentos planteados por el grupo socialista y desde luego compartimos con el grupo socialista la extraordinaria importancia que tiene

vasco y compartimos también con el grupo socialista que es fundamental que este anteproyecto de ley se negocie con los representantes sindicales compartimos por lo tanto también esto en todo caso no se trata de que el parlamento vasco dé o diera en su caso apoyo a cualquier tipo de acuerdo que se alcanzara la responsabilidad del contenido que finalmente tenga esta ley y cualquier otra recae en el parlamento que es el representante de toda la sociedad vasca pero es obvio que el hecho de que se haya producido o se produzca antes una negociación entre ejecutivo y representantes sindicales o sería positivo a nosotros en todo caso nos tocará desmenuzar y estudiar con rigor

las enmiendas que consideremos necesarias una verdadera negociación no se mide por el grado de aceptación de las propuestas de la contraparte sino en base a la buena fe negociadora algo más vidriosa y menos verificable tiene que valorar las propuestas y considerar una verdadera negociación del mismo modo la representación sindical debe realizar un ejercicio de responsabilidad y altura de miras comprometiéndose en la negociación

compartíamos en general la iniciativa socialista la moción finalmente planteada pero consideramos que se queda corta que es muy pobre porque estamos hablando de una ley

del año dos mil catorce y ahora por lo que he podido entender en esa transaccional se pide al gobierno que después de la correspondiente negociación con los sindicatos

venga al parlamento durante el primer semestre del ejercicio dos mil quince por eso digo que tanto la moción como también la transaccional que parece se ha firmado a nosotros nos parece que

se les puede exigir algo más y es lo que nosotros hemos pretendido hacer con nuestra enmienda de

no tenían cabida en la correspondiente enmienda de transacción nosotros observamos que se ha producido un incumplimiento flagrante del calendario legislativo por parte del gobierno vasco esta es una realidad

que ha ocurrido en otras ocasiones que suele ser habitual que ocurra pero que en este caso concreto es evidente y a mí me extraña que ningún grupo parlamentario diga esto es decir se han producido registros de proposiciones de ley de proyectos de ley fuera

fuera de lo que se planteaba en el calendario legislativo tenemos la ley de empleo público tenemos la ley de cooperativas tenemos la ley de aportaciones tenemos la ley de cajas de ahorros tenemos la ley de puertos fuera de plazo se van a presentar si es que finalmente se presentan y prácticamente todos los proyectos de ley que ha presentado este gobierno en esta cámara salvo tres han sido presentados fuera de lo que marcaba el calendario legislativo y a nosotros esto nos parece ciertamente grave y por lo menos upyd plantea denunciarlo y expresarlo en esta cámara por eso nuestra enmienda de totalidad que creo que es exigente que ninguna otra desde luego más que la moción original y más que la transaccional que parece que han alcanzado nosotros proponemos que este parlamento censure al gobierno vasco por el incumplimiento generalizado del calendario que el gobierno elaboró y presentó en su momento y en concreto por el retraso en la presentación del proyecto de ley de empleo público vasco respecto a las fechas comprometidas y recogidas en el calendario legislativo por lo que se refiere a este proyecto de ley proponemos instar al gobierno a llevar a cabo una negociación de buena fe real efectiva y verdadera con los representantes de los trabajadores y a presentar el proyecto de ley de empleo público

de dos mil quince y proponemos que este parlamento eleve su nivel de exigencia a este gobierno e inste a este gobierno a elaborar y presentar

un nuevo calendario legislativo a la vista de los reiterados incumplimientos y retrasos que se están produciendo evidentemente el gobierno tendrá su explicación para cada uno de los retrasos que se han producido tendrá su explicación pero lo cierto es que aquel calendario legislativo que se nos presentó en su momento se ha incumplido reiteradamente y pienso yo que los grupos de la oposición al menos merecen una explicación una explicación

y también que el propio gobierno nos explique qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora y por lo tanto que nos presente un nuevo calendario legislativo con esos proyectos que todavía quedan pendientes de llegar a esta cámara para saber a qué atenernos porque si sigue el ritmo actual por parte del gobierno es posible que finalmente no se presente ni un solo proyecto

que no haya tiempo ni siquiera para debatirlos en fin por esto nosotros seguimos defendiendo nuestra enmienda de totalidad creo que
este parlamento tiene que ser exigente con este gobierno y es lo que hemos tratado de hacer al presentar esta enmienda de totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos

para enmarcar la ley de empleo público y por lo escuchado cuando se sustanció la interpelación es verdad que y además lo recoge la propia ley siete del dos mil siete del estatuto básico del empleado público que la constitución española establece

el estatuto de los funcionarios públicos y que el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno punto dieciocho

del régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones públicas la normativa últimas

y antes de ese dos mil siete las tres normas legales que habían venido constituyendo el núcleo esencial de la legislación básica del estado fueron la ley treinta

la ley cincuenta y tres de mil novecientos ochenta y cuatro incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y más tarde

colectiva para la determinación de las condiciones de empleo pero como decía

la última es la ley siete barra dos mil siete el estatuto básico del empleado público

con la intención de reducir el contenido básico dispuesto por el estado ya que el enorme desarrollo de las administraciones autonómicas y locales exigían un replanteamiento del diseño del régimen del personal a su servicio el régimen de los empleados públicos no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia la administración del estado sino que cada administración debe poder configurar su propia política de personal

y los instrumentos de coordinación por lo tanto ahora hay más espacio

que viene motivada en parte por el estatuto básico del empleado público del dos mil siete

de estos años y de la administración vasca también y no se trata de saltarse las bases como aquí se dijo cuando se sustanció la interpelación

que no haya que respetar la legislación básica del estado pero

que en función de nuestro autogobierno tenemos un amplio margen para elaborar aprobar y desarrollar una ley de empleo público propia actualizada y adaptada a los tiempos y a las características de nuestra administración

no consiste únicamente en una continua reclamación de transferencias competenciales sino en el desarrollo de las herramientas legislativas

y sobre todo en una buena gestión de las mismas por parte de los poderes públicos

político cuando a fecha de hoy existen un buen número de materias pendientes de desarrollo pero por falta de impulso político necesario algunos realizan acusaciones defalsas recentralizaciones y esta materia es un buen ejemplo de esas afirmaciones

de opinión basado en apreciaciones políticas y lo décimos porque aquí se puso como excusa la legislación básica para

y el principal rasgo de la legislación básica en materia de empleo público es la flexibilidad ya que partiendo de los competencias atribuidas por los estatutos de autonomía y la doctrina del tribunal constitucional

desarrollar su propia política de función pública y en desarrollo de lo establecido en el artículo

están obligados a aprobar una nueva legislación de desarrollo de función pública para el personal de su respectivas administraciones

esta obligación además constituye una oportunidad para abordar como decía antes una profunda transformación y modernización del empleo publico también aquí en euskadi

como se dijo cuando se sustanció la interpelación por parte del señor consejero es verdad que en la

ahora es verdad que esos pasos esos trámites se pueden dar de forma o menos rápida y para no hacer solo una critica a este gobierno

que ahora que estamos inmersos en la ley de vivienda quiero

porque según el anterior consejero los trámites eran tan largos y tantos que fue como un vía crucis

y la legislatura acabo sin ley pues esperemos que esta vez no pase lo mismo que algunas de las leyes que están en trámite no tengan que soportar un vía crucis tan largo

por culminarlo porque esta ley de empleo público ya lleva retraso

por petición de los sindicatos pero aparte de esta ley según el calendario del gobierno vasco se tendría que haber presentado otra serie de leyes yo también lo traía escrito es una pena que el señor maneiro no esté aquí porque si no parece que él es el que se arroga las únicas criticas pero

que se anunció en el dos mil trece que trece proyectos se aprobarían en el primer semestre del dos mil catorce siete en el segundo y el resto en el dos mil quince pues bien no se han hecho porque en los dos primeros años de legislatura solo hemos aprobado una ley de las previstas en el calendario legislativo se han remitido diez

que estaban previstas para el dos mil catorce y han sido aplazadas

el consultar a la parte social y nosotros estamos de acuerdo con los proponentes y con el resto de los grupos que esta consulta debe ser efectiva que no debe ser un paripé se dijo aquí que en noviembre del año pasado se produjo esa reunión con los sindicatos y el viceconsejero de función pública y puso de manifiesto que en la mesa general de función pública se habían producido avances

las aportaciones de los sindicatos se iban a tener en cuenta en la redacción del proyecto de ley de empleo público nosotros esperamos que sea así que se tengan en cuenta en la medida

importante como son los representantes de los trabajadores públicos también después de eso se volvió a anunciar que estas medidas

es verdad que se dijo que dado que el volumen de las alegaciones eran muchísimas

por lo tanto nosotros creemos que en vista de las alegaciones puede ser necesario más tiempo pero tampoco creemos que ese tiempo deba ir más allá de junio del dos mil quince es verdad que hay que intentar llegar

hará posible que eso se visualice pero también es cierto y aquí se ha dicho que negociar

admitir inexorablemente todo lo que se proponga y nosotros en eso podemos estar de acuerdo ni tampoco el que porque haya asuntos

vaya a ser muy difícil encontrar un acuerdo o

de conexión al final se demore la aprobación de esta ley porque creemos que

y porque para que a todos nos dé tiempo y también los grupos podamos hacer nuestras aportaciones

no debe ir más allá del dos mil quince por eso nosotros estamos de acuerdo con esas dos premisas que se han puesto aquí de manifiesto una que exista una negociación de verdad y nosotros

pero en cualquier caso la ley esté aquí antes de junio

señorías acabo de censurar en mi primera intervención ante esta cámara que esta ley no se ha presentado dentro del plazo marcado evidentemente el gobierno no ha cumplido con la obligación con el plazo que él mismo se marcó de mandar a esta cámara este de ley de empleo público antes de que terminara el segundo semestre del año pasado y además ya he manifestado en mi anterior intervención

ha incumplido sus promesas manifestadas durante la interpelación que sobre la misma le hice el pleno del doce de diciembre del dos mil catorce y además ha incumplido los compromisos que se autoexigió dentro del calendario legislativo como he dicho el gobierno debe demostrar de una vez

y verdadera en relación con ese anteproyecto de ley tal y como manifestó que quería hacer en el pleno del doce

el consejero el señor erkoreka afirmaba también el consejero en aquella intervención

del propio consejero y yo les digo demuéstrenlo de una vez terminada la presentación de alegaciones

ya a primeros de diciembre solo tenían que responder a esas alegaciones

estamos a cinco de febrero y todavía no han respondido a las alegaciones los sindicatos siguen esperando como estaban esperando ya del doce de diciembre dos meses más tarde vuelvo a repetir es que nada ha cambiado

más celebrada con posterioridad a la última del cinco de noviembre por parte de la mesa general de función pública que no hace falta un calendario de negociación por supuesto que sí porque todo está parado

de diciembre que defender el diálogo no es invocarlo es practicarlo y el consejero de administración pública y justicia

solo ha habido dos reuniones de la mesa general de función pública la del once de septiembre donde se presenta el texto y la del cinco de noviembre donde se presentan alegaciones y a eso solo le han llamado negociación primero prometieron facilitar un borrador a primeros de diciembre donde figuraban las alegaciones

justificándolo sobre la base de que había que realizar un estudio serio de todas las alegaciones presentadas

fecha que el propio consejero manifestó durante su intervención que era contestar a las alegaciones y tener el borrador dentro del mes de enero

ya incumplió el del segundo semestre del año pasado pero a este paso incumplir también el del primer semestre de este año y por tanto solo

promesas y más promesas la falta de negociación con la representación sindical en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de empleo público sigue siendo un clamor público y lejos de palabras y promesas huecas que nos da no dan pasos reales para avanzar

con los sindicatos somos conocedores que la elaboración del proyecto tiene sus correspondientes trámites de audiencia que una negociación nunca es fácil pero hay que realizarla porque además es obligatorio realizarla pero realizarla además de una forma por ello dado la gran importancia y trascendencia que tiene creo la enmienda transaccional que hoy se va a aprobar por la moción presentada es importante y sí que quiero manifestar esa importancia de ese calendario de negociación porque se ve que está parado todo

ni se ha vuelto a dar otra fecha para la mesa general de función pública sí es necesario ese calendario y que además se cumpla venga ese proyecto al parlamento antes del treinta de junio de este año y solo quería

hay un error en la fecha en la que se hizo el monográfico de paro y pobreza que no fue el trece de noviembre fue el siete de noviembre es un mero fallo de fecha pero que se corregirá simplemente y agradecer

eh bildu su colaboración y que hayan firmado esta enmienda transaccional y también agradecer al partido popular que ha manifestado ya que aunque no ha firmado esta enmienda transaccional votará a favor de la misma porque está de acuerdo en la necesidad de la realización

este proyecto de ley de empleo público tiene que venir ya

dentro de este primer semestre del año a esta cámara nada más y muchas gracias

sí muchas gracias presidenta me llama la atención poderosamente que

de eh bildu reivindican la labor que les corresponde a los sindicatos

pero sin embargo no reivindican la labor que nos corresponde a nosotros mismos es decir la labor que corresponde a este parlamento como cámara de control del gobierno vasco esto me llama poderosamente la atención parece que ustedes dan más importancia a la labor que realizan los sindicatos que sin duda es fundamental pero olvidan cuál es la labor que debe realizar este parlamento y desde luego nosotros no estamos en este para aceptar dócilmente todos los incumplimientos reiterados de este gobierno cumplimientos reiterados que ustedes mismos portavoces del grupo socialista y del grupo eh bildu han puesto de manifiesto

acusan al gobierno de incumplir la presentación de este proyecto de ley acusan al gobierno de incumplir el calendario legislativo acusan al gobierno

con los sindicatos pero sin embargo les dan un nuevo plazo

porque lo cierto es que esta transaccional que se va a aprobar al gobierno no le supone ninguna incomodidad porque es evidente que es claramente insuficiente y extraordinariamente pobre lo que aquí al parecer se va y nosotros sinceramente no estamos en este parlamento para aceptar tan dócilmente

reiterados de este gobierno y los incumplimientos también de este consejero que en aquella moción dijo algunas cosas que dijo y que efectivamente están siendo incumplidas por eso no vamos a apoyar esta transaccional que no aporta nada porque se insta al gobierno a negociar con los sindicatos pero es que es obligación del gobierno negociar con los sindicatos

primer semestre de este año cuando teníaque haber presentado este proyecto durante el segundo semestre del ejercicio dos mil catorce tal como se comprometió y por eso

y proponemos que este parlamento censure al gobierno por presentar tarde este proyecto de ley por no haber presentado todavía este

por el incumplimiento reiterado y claro del calendario legislativo que el propio gobierno presentó en su momento voluntariamente en cuyo

los plazos que el gobierno consideró es posible que

ni el grupo socialista ni eh bildu el grupo socialista porque durante la pasada legislatura reiteradamente su propio calendario legislativo y porque si no me equivoco bildu ni siquiera presenta cosa parecida en la diputación foral de gipuzkoa pero señora sánchez basta con decir que usted censura los incumplimientos del gobierno hay que votarlo por eso luego vamos a votar la solicitud de dimisión de la directora general de e i te be ustedes ya lo han defendido en la correspondiente rueda de prensa

tiene que haber un pronunciamiento de esta cámara por eso luego vamos a votar la solicitud de dimisión

la censura por parte de este parlamento a este gobierno por sus reiterados incumplimientos si usted quiere señora sánchez

una posible transaccional que incluya la censura a este gobierno ya digo incumplimientos

no valen las excusas no vale decir que se han presentado muchas alegaciones y que hay que estudiarlas

la culpa no es de los sindicatos la responsabilidad es del gobierno que tenía que haber presentado este proyecto y no ha sido presentado no vale decir que es un proyecto muy complicado

los trámites de audiencia no vale decir que se han presentado muchas alegaciones no vale todo eso se ha incumplido ese calendario legislativo ya digo a día de hoy únicamente tres proyectos de ley se han presentado en plazo todos los demás se han presentado fuera de plazo y todavía quedan muchos proyectos siguen sin presentarse incluido este y en relación a los demás proyectos legislativos no sabemos que es exactamente lo que va a ocurrir por eso proponemos que el gobierno nos explique a día de hoy cual es realmente su calendario legislativo y cuando piensa presentar esos proyectos de ley

negociemos una transaccional en ese sentido ya digo no basta decir

hay que votar esa censura y eso está recogido en nuestra enmienda gracias

gracias de nuevo señora presidenta desde luego a este grupo no se les puede decir que no haya censurado

eso es así es más incluso por parte de este grupo se pidió que algunas de esas normas que estaban establecidas en el calendario legislativo y que nosotros consideramos prioritaria como

precisamente para dar más oportunidades en algunas de las cuestiones que estaban incluidas en ese calendario legislativo nosotros consideramos que debieran de haber sido

y es que hemos denunciado que no estando de acuerdo con el calendario lo acabamos de hacer en el anterior es que ni tan siquiera se ha cumplido porque muchísimas normas que se tendrían que haber presentado no se han presentado yo me imagino que si uno le pregunta al gobierno

que tienen razones poderosísimas para que esas normas hayan podido presentar a tiempo razones que por otra parte seguro que en otras instancias se le pueden dar pero que no son compartidas y son sujetas a críticas de la misma manera

nos invaden las competencias a que no nos dan más competencias pero con las propias se gestionan de forma absolutamente

y produce las consecuencias que produce y que está haciendo que esta comunidad autónoma sea la que tenga los peores índices en cuanto a la creación

al resto pero parece que es más difícil gobernar y tomar decisiones y después hacerse responsable de esas decisiones se decía aquí que para qué

era necesario un calendario de negociación

que se ponga de manifiesto cuál es y yo además creo que es bueno que exista ese calendario

que se establezcan una serie de plazos en los que va a haber esa serie de reuniones porque también eso implica que no se dilate el procedimiento

y que cuando lleguemos a mayo de este año se diga no es que es necesario volver

reuniones se intente llegar a un acuerdo yo lo decía en mi primera intervención es verdad que la negociación está establecida ya por ley

de los propios procedimientos que la ley establece para la elaboración de las disposiciones de carácter general

ni responder a las alegaciones significa que se tiene que estimar absolutamente esa alegación a veces se puede responder a la alegación diciendo que esa alegación por la razón que fuera pertinente en ese momento no puede ser aceptada pero es verdad que la negociación tiene que ser una negociación de verdad y que no puede ser

que el calendario es bueno que exista como es bueno que haya un compromiso pero por parte de todos los grupos en esta cámara de que se traiga la ley antes de junio del dos mil quince porque aquí se ha dicho que es importante la ley pero no cualquier ley pero también hay que decir que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno

una ley tan perfecta en la que haya tal grado de consenso que al final no llegamos ni a debatirla porque

para que los representantes de los ciudadanos que somos nosotros podamos debatir la ley las aportaciones oportunas luego nosotros vamos a aprobar no sé si aportará más o menos yo en cualquier caso le digo que si se hubiera planteado lo suyo hubiéramos

para los sindicatos sino para el propio gobierno para que luego los sindicatos no puedan dilatar más en el tiempo la negociación de la ley y que se presente antes de junio de este año también es importante sobre todo para que a nosotros

vuelve usted a echar en cara al gobierno vasco que no ha cumplido con el plazo

está paralizada lo cierto es que habría sido más fácil presentar un texto cumplir simplemente las formalidades que dice la ley que debe cumplir

disposición general a la hora de su elaboración y remitir al parlamento dicho texto pero no ha sido así

un proceso de negociación en el que se dio

a una participación amplia una participación extensa de agentes interesados en hacer alegaciones y aportaciones al

de hecho como lo hemos citado anteriormente ha habido

alegaciones de entidades y agentes de distintos colores

el diálogo es practicarlo y estamos muy de acuerdo

que hace también tenemos muy presente que hace dos años estábamos

remitido por el anterior gobierno socialista que no contaba con ningún tipo de alegación

de hecho no consta que haya habido ninguna aportación ninguna alegación

y en cambio en esta ocasión pues contamos con mil doscientos cuarenta y uno alegaciones

y muchas de ellas se van a incorporar al texto que finalmente vamos a tener que debatir en esta cámara nosotros no hemos dicho que no sea

de negociación decimos que ya existe ese calendario que el proceso de negociación ya se está dando y que esta iniciativa

llega tarde porque como he dicho anteriormente ha existido este procedimiento de negociación ha existido este calendario

en la respuesta que le dio a la interpelación que le planteó lo relató con todo detalle y porque estamos ya a nuestro entender en la fase antes de que se apruebe definitivamente el texto que vamos a tener la oportunidad de debatir en esta cámara por lo tanto nosotros vamos a

de la enmienda a la totalidad que presentamos eta besterik gabe mila esker eskerrik asko

por todo ello consideramos además que la actual directora general no debe seguir más

en dos años solo ha aportado conflictividad ha perdido la confianza de los representantes de los trabajadores y ha perdido y sigue perdiendo la confianza de la audiencia y de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta cámara

ha abordado una cuestión pendiente es cierto la de los trabajadores indefinidos no fijos que surge a raíz de decisiones irregulares

cuando el señor ortuzar era el director general del mismo ha afrontado el reto cierto pero desde nuestro punto de vista le ha dado la respuesta más incorrecta posible haciendo pagar a un colectivo concreto de trabajadores y trabajadoras del ente las consecuencias de una mala gestión y de una trasgresión de la ley en su momento no obstante hay que reconocer

tiene razón cuando afirma que el consejo de administración le dio autorización para despedir a parte de esos trabajadores

de dos mil catorce dice concretamente el consejo de administración autoriza a la directora general a realizar una convocatoria de empleo para

de cubrir de forma definitiva cuarenta y nueve plazas que se consideran indispensables para garantizar las necesidades actuales y futuras del proceso productivo así como amortizar treinta puestos de trabajo en el marco del proceso de regularización de los indefinidos no fijos en los términos recogidos en la memoria

este es el literal que obtuvo catorce votos a favor en el consejo de administración el de los consejeros propuestos por pnv por euskal herria bildu euskaltzaindia

dos votos en contra los de los consejeros a propuesta del partido popular y cuatro abstenciones

y el representante de la unión de consumidores y me he querido ceñir

para que no haya lugar a malas interpretaciones voy a repetir los argumentos que expuso en aquel consejo mi compañera la señora mendia y que después hemos repetido en esta cámara y en otros foros hasta la saciedad argumentos que son igual de válidos hoy como hace diez meses

voy a reproducir su intervención en la que comenzaba diciendo que la decisión que se estaba tomando adolecía

en e i te be y el condicionamiento de la convocatoria pública de empleo

del plan estratégico como el bilingüismo que no va a ser posible cumplir en este mandato sin una valoración previa de todos los puestos de trabajo y sus diferentes niveles de crecimiento del euskera reprochó así mismo la señora mendia

reflejaba categorías profesionales genéricas y no se indicaba el criterio que se va a seguir para elegir un puesto de trabajo u otro para la convocatoria de empleo o cuáles van a ser amortizados y las consecuencias que esa decisión implica para los afectados cuando todos ellos accedieron a eusko irratia después

pruebas de acceso al ente no reguladas por una convocatoria específica de empleo público pero sí con medidas o con pruebas

directa del arrendamiento de servicios o del contrato mercantil recordó también la señora mendia que la consideración de indefinido no fijo supone reconocer

permanentes de la empresa y por lo tanto forman parte de la plantilla estructural

públicas de empleo para estabilizar y reducir la interinidad en la administración pero no podíamos respaldar y así lo hicimos una convocatoria de empleo

mejor dicho por las dudas jurídicas que presenta la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores algo fundamental en un proceso de este tipo

de puestos de trabajo públicos y va a conducir además y condujo de hecho

de radio televisión pública de futuro esa fue la posición socialista

y esta es la posición socialista el cinco de febrero del dos mil quince

con convocatorias de empleo que estabilicen plantillas pero no las que destruyen empleo estamos de acuerdo con una adecuación de recursos humanos a necesidades presentes y futuras del servicio público que se presta pero no a prescindir de esos recursos humanos estamos de acuerdo

y el diálogo social estamos en contra de que los gestores públicos propicien una conflictividad que había podido evitarse y de paso una merma en la prestación del servicio y en la calidad del servicio de radio televisión vasca ahora

se ha destapado que todos los argumentos ofrecidos en los últimos meses por parte de la dirección y quienes apoyaron aquella convocatoria de empleo han resultado un engaño

desde el principio es un ere descubierto y que un ere puede ser un instrumento legal pero no es desde luego un instrumento de creación de empleo como su propio nombre indica y como nosotros lo hemos venido diciendo reiteradamente se ha convertido de paso la palabra del propio lehendakari quien

garantizo el mantenimiento del empleo público que afecta a e i te be

no va a pasar a pesar de los ajustes lo que está pasando en otras televisiones autonómicas o en la televisión española garantizo

que eso no va a suceder y décimos que la sentencia es una excusa porque dicha sentencia como bien explica el informe jurídico establece aquello a lo que está obligado e i te be

la sentencia lo que dice es que si antes la directora general preveía despedir a los trabajadores afectados con cero euros de indemnización

la sentencia no dice que tenga que despedir a indefinidos no fijos ni que un ere sea haga sobre un colectivo concreto

y la reforma laboral del señor rajoy se lo permita eso no dice la sentencia eso es lo que se puede evitar si la directora general hubiese atendido en su momento a lo que la mayoría de los representantes de esta cámara

que retire el ere que presente un plan sobre las necesidades actuales y futuras del ente que contraste las competencias de todos los trabajadores que ocupan plazas estructurales y que defina los objetivos a conseguir y consensue su actuación con los representantes de los trabajadores

de dos mil catorce hoy ya no hay dudas legales aquellas que se expresaron como he dicho en aquel consejo de administración de abril de dos mil catorce ya no son son certezas hemos estado diez meses trasladando estas dudas y queriendo solucionar a través de iniciativas parlamentarias aquel lío que nosotros considerábamos que había sido un entuerto han sido constantes por nuestra parte todas estas iniciativas como digo tratando de resolver

un problema en el que nos había metido la dirección y quienes apoyaron aquella resolución

hoy las dudas están despejadas hay un ere como decíamos y la convocatoria de empleo no consolida ni mucho menos crea puestos ni regulariza a los indefinidos no fijos

se refieren a la capacidad de relación no ya de la directora sino del propio gobierno vasco y tenemos que apelar al gobierno porque como ya he dicho el propio lehendakari comprometió su palabra en relación al mantenimiento del empleo estructural porque el propio gobierno en otras áreas de la administración

que va a regularizar indefinidos no fijos con procedimientos distintos precisamente al que se ha hecho en el ente de radio televisión vasca eso es lo que aquí se ha anunciado

a cabo también en e i te be que todas estas iniciativas vayan dirigidas a que esos trabajadores consoliden sus puestos lo que se

se debía haber hecho en e i te be y porque al final el gobierno

de la situación y si no la aborda y resuelve solo sembrará incertidumbre en el resto de los trabajadores del sector público que no podrán confiar

sobre el futuro de sus puestos de trabajo los socialistas pedimos

directamente a la directora su dimisión la pedimos

no salió aquella petición por razones que todos conocemos ni la afectada

como el gobierno hasta ahora no ha querido abordar el problema y darle solución adecuada

la solicitud del cese de la directora y del director de recursos humanos porque consideramos que son los responsables directos

e inestabilidad generada en e i te be hemos firmado

que considero recoge las líneas generales que pueden ser las líneas básicas que pueden ayudar a enmendar aquello que se comenzó

los cuatro puntos de esta enmienda recogen sino todos la mayoría de ellos el consenso

gracias de nuevo señora presidenta bueno pues asistimos a un capítulo más de la situación

llevan viviendo setenta y nueve trabajadores de radio euskadi es en esa fecha

como se ha dicho aquí con dos únicos votos en contra entonces parecíamos los raros pero los dos únicos votos en contra del partido popular de esta parlamentario y del otro representante

de cuarenta y nueve plazas esta oferta la directora general la confirma a una agencia de comunicación el siete de marzo a través de una entrevista

diez días más tarde de que lo confirma esa agencia de comunicaciones cuando se lo comunica a los afectados ya ve que prefiere contárselo primero a los medios y eso demuestra

la plantilla en general y por estos trabajadores en particular una ope que lo hemos dicho desde el principio y lo vamos a continuar diciendo

estar destinada a la creación de empleo y esta está destinada a la destrucción del mismo fue justificada desde la dirección de e i te be por la necesidad de regularizar determinados contratos eso es lo que se nos ha dicho desde el principio pero desde el principio nosotros también hemos dicho que esa regularización ya se había producido que la inspección de trabajo les había calificado como indefinidos y formando parte de la plantilla estructural de ente

no fijos se le puede poner los apellidos que se dé la gana pero la seguridad social y la justicia dijo que formaban parte de la plantilla del ente por eso diez meses llevan los trabajadores denunciando que no había forma de despedirlos que son trabajadores indefinidos que el apellido no fijo puesto desde la dirección pero que la única forma de despedirlo era un ere y aquí se ha negado por activa y por pasiva y este grupo lo ha dicho desde el principio que era un ere encubierto

parece que la dirección al señor uribe etxebarria también le pregunto

quiénes teníamos razón desde el principio que esto era un ere en cubierto se ha dicho

por la forma en la que habían entrado los trabajadores del ente estos trabajadores en el ente pero hemos de decir lo mismo que hemos dicho en todas la ocasiones que cuando entraron

que fue la responsabilidad de los equipos directivos de entonces elegir la fórmula de que estos trabajadores entrasen

ha sido responsabilidad de las sucesivas direcciones de eitb

entraron gracias a un centenar de contratos irregulares firmados en la época

la inspección de trabajo y la justicia lo regularizó y que por tanto son empleados de pleno derecho de e i te be y lo son por la incompetencia de las sucesivas direcciones del señor ortuzar del señor beloki del señor camino del señor salgado

por la dirección de entonces y la de ahora y de todo eso tiene la culpa los trabajadores los que tienen que pagar ahora son los trabajadores de ese descontrol y de los errores

y además es que algunos les han querido colgar

y entraron a través de becas en muchas ocasiones de becas en el último curso

de navarra y han estado como digo durante mucho tiempo trabajando allí algunos llevan diez otros quince y otros incluso veinte años

por parte de alguno que es que eran su situación de provisionalidad pues yo vamos de verdad no sé si es que es un problema con el castellano pero miren la definición de provisional

creo que para todos los que hablamos castellano es lo contrario a ser provisional y hay que contar también más cosas

los contratos de artistas de e i te be que han sido denunciados por la inspección de trabajo los veinticuatro trabajadores cedidos ilegalmente a por e i te be

la ope ahora recurrida el ere que a todas luces desde el principio dijimos que se iba a producir y aquí con todo esto nadie asume responsabilidades nadie

trabajadores a los que se le intenta hacer cargar con las consecuencias y a los que ahora se intenta

ahora se vayan a la calle eso es lo que significaba esta ope y se va adespedir

parte de e i te be pero esto que ahora parece que se ve claro hace diez meses no se veía tan claro

y se aprobó la ope y se pretendía echar a la calle

a setenta y nueve trabajadores y saben lo peor

que todos sabían esto desde el principio porque los trabajadores se pusieron en contacto con todos los grupos con todos con el partido nacionalista con los representantes de bildu conmigo y con el partido socialista con todos y a todos nos contaron lo mismo

se lo contaron y les dijeron lo que iba a pasar

y dijeron que no que no había ningún ere y que se les podía despedir bueno pues ahora que ya se ha descubierto

ha pasado a ser un ere descubierto van a pedir disculpas a esos trabajadores

las bases están impugnadas está en la justicia y le dijimos a la consejera nosotros pedimos la comparecencia de la señora consejera que luego al final no nos contestó ella mucho la verdad

era la consejera porque le queríamos preguntar si tenían un plan b

si la justicia tumbaba esta ope iban a asumir

más los cuarenta y nueve que en su caso aprobase la ope se dio la máxima seguridad yo si fuera

despacho de abogados iría al que les asesora a ustedes porque la seguridad es absoluta de que no va a pasar nada que la justicia

esa seguridad pero bueno yo no lo tengo tan claro y veremos qué pasa

y si dice que esas setenta y nueve personas forman parte de la plantilla de e i te be y que tienen que ser readmitidas y qué pasa con los que aprueben la convocatoria qué van a hacer le van a dar la plaza y luego se la van a quitar

y ahora se dice que las cuarenta y nueve plazas son fruto de un análisis riguroso de las necesidades de profesionales para las distintas emisoras de e i te be

es asegurar la sostenibilidad de la radio pública vasca en particular y de e i te be en general bien

y la tele es posible hacer una tele también con menos personas

y mientras estamos hablando de esto claro no hablamos de cómo va la radio

de una tele con unos índices de audiencia cada vez más bajos y con una línea

hacia el mismo sitio ahora sí se habla de sostenibilidad y necesidades de la radio y ya les repito lo que he dicho siempre este grupo ha dicho hasta la saciedad y por qué solo se analizan las necesidades de la radio por qué no se analizan las necesidades de todo el ente por qué no se estudia el presupuesto de todo el ente toda la plantilla

es posible optimizar esa plantilla y a lo mejor prescindir de trabajos realizados por productoras y de esta manera no hay que despedir a nadie

más fácil se decide que la plantilla es excesiva por qué no se dice claramente y se asume las consecuencias de esa decisión

y asumir las consecuencias de esa decisión no hablar ni poner subterfugios ni hacer trampas con el lenguaje escoger el camino más fácil y luego hablar de ere

un ere que lo que hace es mandar a la gente a la calle que es lo que existía desde el principio

regularización del personal traducido despido de setenta y nueve personas ahora se le llama ere instrumental traducción despido de setenta y nueve personas eso es y desde luego
ha dado lugar a la mayor conflictividad que ha venido nunca sufriendo el ente llanos anderea amaitzen joan sí voy terminando

gobernar es tomar decisiones y asumir las consecuencias de la misma y desde luego las decisiones que ha tomado la actual dirección de e i te be no han podido ser perores pues que asuma las consecuencias de la misma nada más muchas gracias

desde el pnv por responsabilidad institucional manifestamos nuestro pleno apoyo a la directora general de e i te be y a su equipo

electoralistas hipócritas y oportunistas porque este equipo de e i te be está desarrollando un buen trabajo profesional consiguiendo los objetivos económicos y comunicativos de servicio público marcados y por lo tanto pensamos que no existen razones serias y objetivas

ustedes saben que la convocatoria pública de empleo que acaba de culminar y que algunos quieren poner en cuestión se diseñó hace más de un año y se negoció con la parte social fue fruto de una negociación muy larga e intensa con los dos sindicatos mayoritarios

y también con los miembros del consejo de administración de e i te be así como ha comentado el señor unzalu el veintinueve de abril

de dos mil catorce el consejo de administración aprobó la cpe el acuerdo

autorizaba a la dirección una convocatoria pública de empleo con el fin de cubrir cuarenta y nueve plazas fijas y amortizar treinta y nueve puestos de trabajo en el marco del proceso de regularización de los indefinidos no fijos

como se ha dicho a favor cuatro abstenciones y tan solo

señorías cuando votamos tanto los votos favorables como las abstenciones aunque por otras razones de las que ya hablaremos o los votos en contra de los representantes del partido popular todos fuimos muy conscientes de lo que votábamos por qué lo votábamos y cuáles eran las razones de esa convocatoria de empleo su filosofía y objetivos los representantes nombrados por el partido socialista se abstuvieron

en contra y la razón fundamentalmente argumentada por la señora mendia en aquella ocasión fueron dudas en cuanto a la seguridad jurídica poder organizar una convocatoria pública de empleo dadas las restricciones establecidas por el gobierno del señor rajoy ustedes votaron en contra señora llanos efectivamente pero no me venga a mí a decir que ahora quieren convertirse en los campeones de la defensa de los derechos de los trabajadores y menos de e i te be

lo que les gustaría y prueba de ello es las posteriores declaraciones y votaciones que han hecho en este parlamento lo que les gustaría

dentro de e i te be y reducirla a la mínima expresión esas son sus verdaderas intenciones

a nadie prueba de ello también es el recurso del señor urquijo no por la defensa de los trabajadores sino por mermar o cercenar

del partido socialista las capacidades de autogobierno vasco en este caso en materia laboral y de convocatoria de ofertas públicas de empleo se trataba con la cpe de dar una situación a una situación producida

poco después de iniciarse la legislatura socialista señor unzalu cuando por sentencia judicial

y ustedes no hicieron nada y luego volveré sobre eso y volveré también sobre la actuación del señor ortuzar que está suficientemente explicada en esta cámara y a la cual actuación el año dos mil tres todos desde la izquierda abertzale pasando por el partido socialista el partido popular dieron sus absolutas

no está la señora celaá pero bueno fue la que intervino en aquella ocasión los objetivos de la cpe son conocidos y sabidos consolidar

en cuarenta y nueve puestos consolidarlos a través de un concurso bajo los principios de mérito capacidad e igualdad reforzar el bilingüismo en las radios de e i te be modernizar la gestión de las radios y garantizar su habilidad y sostenibilidad futura

se ha desarrollado con normalidad y eso es importante subrayarlo y lo digo porque ante las lógicas y habituales reclamaciones que suelen existir en un proceso de este tipo todas las reclamaciones insisto que todas han sido rechazadas por unanimidad por el tribunal evaluador que lo componen entre otros

a cabo la ope y no confundamos interesadamente ni manipulemos interesadamente y mezclando la ope con el ere

porque en el transcurso de todo este proceso como ustedes perfectamente saben y conocen concretamente a finales de junio el pleno de lo social del tribunal supremo cambió la doctrina jurisprudencial

esa sentencia no modifica la naturaleza de los indefinidos no fijos ni tampoco la plena validez de la convocatoria de empleo solamente incide

que no hubieran obtenido plaza en la convocatoria de empleo por lo tanto como ustedes saben perfectamente nos encontramos ante un hecho sobrevenido e inesperado eso del ere en cubierto señora llanos no es

es una sentencia judicial que implica utilizar como herramienta un ere para finalizar adecuadamente una de las partes de la convocatoria pública de empleo es por lo tanto un aspecto estrictamente puntual instrumental no concebido inicialmente

que nadie se lleve a engaño nadie todos tenemos la información suficiente

no utilizar el ere como instrumento de extinción de los contratos puede poner en peligro la propia convocatoria de empleo que nadie se haga trampas en el solitario

y en contra de este ere instrumental y puntual eso es imposible es inviable

ha estudiado efectivamente a fondo todas las posibilidades y todos ustedes saben perfectamente que el ere viene impuesto legal y jurisprudencialmente

el ere supone ofrecer mejores condiciones que una mera extinción individual e individualizada de los contratos indefinidos no fijos y por qué digo esto lo digo porque las indemnizaciones por extinción y de individual son de ocho a doce días por año trabajado

exige al menos una indemnización de veinte días por año trabajado porque el ere exige un documento justificativo por parte de la dirección de e i te be que a de presentarse ante la autoridad laboral y porque finalmente el ere exige una negociación real con los sindicatos representativos todo eso exige el ere y no la extinción individualizada de los contratos

han sido fruto efectivamente señora llanos de un análisis riguroso de las necesidades profesionales para las distintas emisoras de e i te be

de esta manera se van a situar en la onda de los cambios en los que está inmerso el sector y que apuntan en la dirección de una radio televisión multimedia avanzada además todo esto contribuye al objetivo de una radio bilingüe acorde con la demanda de la sociedad vasca

hemos firmado finalmente una transaccional con el grupo socialista donde se recogen además de otras cuestiones fundamentalmente las que creo que las más importantes por un lado la posición de este parlamento vasco contraria al ere de extinción planteado en eusko irratia y la solicitud de dimisión de la directora general de e i te be y evidentemente aquí

a lo que quiera dar nosotros vamos a explicar cuáles son las razones por las cuales pedimos nuevamente la dimisión de la señora iturbe ya digo que

en todo caso creo que se va a producir finalmente una mayoría parlamentaria que va a exigir la dimisión a la directora general de e i te be

planteada y puesta a la luz durante

nosotros hace años que venimos pidiendo un verdadero redimensionamiento del ente público cosa que estaba incluida en nuestra enmienda

que suponga su reestructuración su redimensionamiento y su adelgazamiento pero eso no significa que vayamos a avalar los despidos que se van a producir

del ere que propone ahora la dirección los argumentos ya han sido planteados por otros grupos en concreto el partido popular y el partido socialista de euskadi nosotros lo que hemos pedido siempre y queremos es la reestructuración global de e i te be para que tenga las cadenas y las emisoras necesarias para que sea un servicio público y sobre todo que sea un servicio público de calidad y para nosotros es vital la profesionalidad la pluralidad y la imparcialidad en toda la política general de e i te be en su programación

y seguimos defendiendo los mismos objetivos que hemos venido defendiendo en los últimos años

un redimensionamiento del ente de verdad previo estudio riguroso y análisis que analice las necesidades de plantilla pero sin trampas

la reducción de su estructura que pueda convertirse de verdad en un servicio público

y que se respeten los principios de profesionalidad pluralidad imparcialidad e independencia nosotros vamos a pedir otra vez aquí la dimisión

nuestra razón fundamental más allá del ere que también se incluye entre las razones por las cuales pedimos su dimisión es que la dirección general de e i te be está al servicio del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco para nosotros lo fundamental y esta es la razón primordial por la cual planteamos la dimisión de hecho ni el partido popular ni el partido socialista en sus iniciativas

la dimisión de la directora general nosotros sí y ha sido principalmente por este asunto por haber incumplido reiteradamente

los medios públicos de comunicación y esto señor uribe no es un hecho sobrevenido o inesperado sino que es algo perfectamente se ha vulnerado reiteradamente los principios de objetividad informativa de neutralidad ideológica de respeto al pluralismo político de veracidad

y de profesionalidad históricamente ya sabemos qué ha pretendido ser y qué ha sido e i te be una televisión nacionalista para nacionalistas un ente que ha tenido como objetivo convertir a los ciudadanos vascos

que ha trasladado una visión parcial y parcelada de la sociedad vasca que ha informado de forma profundamente sectaria y que no ha respondido al interés general del conjunto de la sociedad el ere propuesto es una razón más para pedir la dimisión de la señora iturbe pero lo cierto es que

al menos nuestras razones se acumulan en el tiempo se amontonan en primer lugar fue la implantación del mapa del tiempo en los informativos de dar la sensación y trasladar la idea de que vascos navarros y ciudadanos del sur de francia formamos parte de una misma comunidad política los informativos convertidos en monográficos de la causa nacionalista de la causa y del programa nacionalista

al mundo nacionalista el relato de los hechos ocurridos en navarra y en el sur de francia para trasladar esa idea de gran euskal herria

y todo esto mientras se oculta se pospone o se reduce a la mínima expresión toda aquella información que pueda perjudicar al partido nacionalista vasco

los programas de debate o de tertulia donde los presentadores son cualquier cosa pero sobre todo y ante todo nacionalistas donde los moderadores son cualquier cosa pero sobre todo y ante todo mayoritariamente nacionalistas los moderadores no son moderadores en e i te be

y a menudo participan en las tertulias y programas como uno más que apoya la causa sagrada del nacionalismo el penúltimo hecho que hemos podido denunciar ha sido la inclusión de un tertuliano que fue miembro de la banda terrorista eta nada más y nada menos estas cosas son las que ha venido pasando en e i te be durante todo este tiempo la distribución de los tiempos entre las diferentes sensibilidades políticas de euskadi

sobre la que se insiste cómo se tratan los temas el momento en que se tratan los temas el lenguaje que se emplea el modo de narrar lo que se cuenta los moderadores los presentadores las preguntas que se realizan los comentarios es un cúmulo de circunstancias que están a la vista

e i te be ya digo que lo último ha sido la incorporación de un ex miembro de eta como tertuliano en ese equilibrio

entre el nacionalismo moderado y nacionalismo violento para e i te be españa es un país extranjero y el estado español un estado opresor cuando se informa de lo que ocurre en el congreso de los diputados a los vascos solo nos representan o el pnv o amaiur únicos partidos políticos vascos

de e i te be ha habido algún otro capítulo en los últimos tiempos no hay eurodiputados vascos más allá de los eurodiputados vascos nacionalistas

no hay partidos políticos más allá del partido popular podemos partido socialista y a partir de ahí los partidos políticos en fin es todo un despropósito que nosotros no vamos a aceptar

los datos de audiencia que son ciertamente lamentables y la ope y el ere

ya expresados por algunos de los portavoces que han intervenido el asunto es muy sencillo nosotros no estamos dispuestos a avalar la labor realizada por la señora iturbe en todo este tiempo al revés justo lo contrario lo seguimos denunciando y pedimos su dimisión no estamos dispuestos a que los ciudadanos vascos paguemos ciento diez millónes de euros anuales para que sea el servicio que ayuda permanentemente al gobierno y al partido nacionalista vasco no estamos dispuestos y para nosotros esto es lo fundamental de la cuestión también el ere pero todo lo demás

todo lo demás y el hecho de que e i te be se haya convertido definitivamente en un instrumento al servicio del nacionalismo decía el señor uribe etxebarria que no hay razones objetivas para pedir la dimisión es su opinión lógicamente cuando tiene una televisión y una radio que está a su servicio es lógico que en su mente y en su cabeza tenga la idea

razones múltiples hay razones que se han ido acumulando en el tiempo

es posible que esta cámara finalmente vote la dimisión de la directora general de e i te be

que este parlamento pide la dimisión y por lo tanto que hay una mayoría social que

de e i te be que reniega de los postulados que ha venido defendiendo y de la gestión que ha venido realizando también la propia dirección ya digo cada partido cada grupo político tendrá sus razones para pedir la dimisión en nuestra opinión lo importante en el pleno de hoy es que nuevamente se va a pedir en este caso por mayoría la dimisión de la señora iturbe

en todo caso todos estamos de acuerdo en que la señora